administrazioarentzako y una segunda cuestión señor erkoreka al hilo de la interoperabilidad podemos contemplar la idea

puedan llegar en un marco temporal no demasiado lejano le pregunto esto porque creo que debemos evitar que el reparto competencial obligue

y entiendo que el avance hacia la ventanilla única es una necesidad que la ciudadanía reclama a la administración eskerrik asko

zerbitzu emaitza desde la aprobación de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que ocurrió el año dos mil siete

los datos e informaciones que obren en poder no ya de esa administración sino que obren en poder del conjunto de las administraciones públicas y la ley establecía ya en el año dos mil siete insisto a este respecto que para hacer

era imprescindible que las administraciones públicas interactuaran entre sí establecieran los mecanismos de interoperabilidad necesarios para que el acceso a la información mutua el intercambio de información se pudiera producir a través de medios electrónicos

y siempre desde el máximo respeto a los datos personales de los ciudadanos que para acceder a ellos es preciso el permiso la autorización de la

el gobierno vasco está desde hace ya tiempo empeñado en hacer efectiva esta previsión de la ley en garantizar el cumplimiento efectivo en euskadi de este derecho y desde hace ya bastante tiempo estamos trabajando intensamente con el resto de las administraciones públicas que operan en euskadi con la administración general del estado

para poner en marcha instrumentos de colaboración interinstitucional que hagan posible la afectividad de este derecho con esta finalidad hemos suscrito ya varios convenios

la prestación mutua de servicios de información administrativa y gestión electrónica entre unas instancias y otras

y medianos los que disponen de recursos informáticos propios

que van a ser ciertamente estratégicos porque suponen una ampliación cualitativa de los que venían

y van a ampliar la prestación de servicios y van a establecer las bases para que en el futuro la intercomunicación y el intercambio de datos pueda ser mucho más efectivo y mucho más amplio sin necesidad de

para que se haga una idea exactamente de lo que esto viene a suponer desde que se puso en marcha el sistema en términos todavía incipientes parciales y muy fragmentarios

más de cuatro millónes de datos lo cual significa que se ha ahorrado a los ciudadanos y ciudadanas cuatro millónes de gestiones que tenían que haber hecho personalmente

a partir de la suscripción de estos convenios con las diputaciones y la puesta en marcha los mecanismos que se contemplan ahí estas cifras se van a multiplicar de manera exponencial y estaremos no en el terreno todavía de la

pasos cualitativos hacia ese horizonte de la ventanilla única que tiene que ser el objetivo creo yo irrenunciable de las administraciones públicas

unas y otras hace posible el intercambio electrónico de datos siempre en atención y en servicio al ciudadano y a la ciudadana que es

ezin dela kartzelan egon hau guztiz bateraezina dela bere gaixotasunarekin la enfermedad grave e incurable que padece el preso

en términos humanitarios este parlamento ya se ha posicionado solicitando

sin rechazar esta solución reafirmándonos en la

hoy hacemos otra propuesta porque tenemos otra prioridad

vendrá a atender un juicio por unas causas menores

a juzgados de bilbao no está confirmado pero puede ser que ha sido ya conducido desde alcalá meco

que esté ahora en una cárcel aquí en euskal herria sin duda no se puede confirmar pero la conducción no le habrá resultado fácil no le habrá resultado cómoda en el estado en que se encuentra debemos de impedir que una vez terminadas las diligencias judiciales en bilbao le vuelvan a llevar de vuelta a la dispersión

a la desprotección lejos de la atención de sus médicos lejos de la atención de su familia y de sus seres queridos oso kaltegarria izango litzateke

el gobierno vasco nunca ha dejado de hacer todo lo posible para proponer y buscar soluciones humanitarias para las personas presas enfermas en base a las posibilidades del marco legal lo hacemos con discreción y también en este caso de ibon iparragirre

sabe que en estos días lo estamos haciendo además con especial intensidad manteniendo contactos y gestiones con el objetivo de mejorar su situación lo antes posible

saludamos también a los representantes del frente polisario que nos acompañan hoy en la cámara

el número de familias que no cuentan con ayuda económica en momento de necesidad se ha incrementado hablamos de personas de familias con serias dificultades para llegar a fin de mes

y hablamos de personas que llevan demasiado tiempo en el paro y que han agotado su prestación por desempleo los socialistas defendemos el sistema público de protección social

de unos mínimos ingresos que cubran las necesidades básicas en momentos de necesidad y si bien es cierto que en euskadi la red de solidaridad institucional

muchas personas se están quedando fuera del sistema en el pleno monográfico sobre empleo y pobreza celebrado el siete de noviembre aprobamos entre otras resoluciones revisar el conjunto de requisitos de ayudas y prestaciones sociales a fin de evaluar posibles consecuencias lesivas para personas potencialmente beneficiarias y a no considerar inmueble a los efectos de la denegación de la prestación aquellos inmuebles distintos de la vivienda habitual es decir

y en este sentido los socialistas registramos a primeros de año una proposición no de ley relativa a la adecuación del decreto regulador de las ayudas de emergencia social precisamente

que teniendo justificada la necesidad se están quedando fuera por situaciones que la crisis económica ha destapado este decreto impuso en su día unos estándares patrimoniales para impedir el uso fraudulento de las ayudas de emergencia social

dejan abierta la puerta a la exclusión porque una herencia compartida en un inmueble un terreno una lonja que no se acaba de vender

restringiendo el acceso al sistema a personas con auténticas emergencias y que no tienen liquidez personas

pero que no pueden vender y que no tienen dinero para afrontar los gastos de primera necesidad y los gastos propios de la vivienda por eso los socialistas propusimos modificación del decreto que se gire el criterio de propiedad al de liquidez con todas las cautelas que el gobierno considere

regulador de las ayudas de emergencia social es competencia única y exclusiva del gobierno pasados ya ocho meses desde la aprobación de esta iniciativa y cerca de concluir el año dos mil quince

del decreto cuatro barra dos mil once de las ayudas de emergencia social para dar respuesta a aquellas personas que teniendo justificada la necesidad se están quedando fuera

aldatzeko pausuak emateko bi mila hamabostean atendiendo al requerimiento parlamentario

una reunión de la comisión interinstitucional para la inclusión social toda vez que el inicio de cualquier tramitación del expediente concerniente a dicho cambio legislativo requiere

desde eudel con fecha quince de mayo de dos mil quince se envió escrito al gobierno vasco para indicar que sus representantes no podrían asistir a la reunión por estar los responsables en pleno

teniendo en cuenta que las modificaciones al decreto afectan directamente a la gestión y que se realiza desde los ayuntamientos al no poder contar con su presencia se procedió

tan pronto fuese posible eudel solicitó al departamento realizar una reunión técnica con los nuevos representantes municipales reunión que tuvo lugar el pasado siete de octubre y vamos a proceder de inmediato a convocar nuevamente a la comisión interinstitucional para la inclusión social esperando que la reunión

del expediente de modificación del decreto cuatro barra dos mil once regulador de las ayudas de emergencia social no obstante le puedo asegurar que hemos trabajado en la reforma de los contenidos para someterlos a su debate y aprobación tan pronto sea posible

de empleo y los objetivos que se ha fijado en una reciente comparecencia

en dos mil catorce en relación al plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis nos decía el consejero de empleo y políticas sociales que nuestras cifras de intermediación son muy bajas un dos coma seis por ciento y el objetivo es el cinco por ciento pero que no se iba a cumplir gobernu honek ezin ditu

erronkak betetzen este gobierno es incapaz

seguía el señor consejero en la misma comparecencia tenemos una asignatura pendiente en esto y en lanbide la mayor preocupación es la intermediación laboral

komenigarria izango litzateke gai honetan gauza batzuk argitzea se fijan unos objetivos que son incapaces de cumplir son incapaces este gobierno

y qué criterios la ha llevado a este gobierno que usted preside a renunciar al cumplimiento de los objetivos en materia de empleo de intermediación laboral uno de los principales problemas de los ciudadanos vascos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora garrido el empleo sigue siendo el objetivo central de este gobierno y no hemos
al cumplimiento de los objetivos planteados y de hecho los estamos cumpliendo le recuerdo que el empleo está creciendo en euskadi por primera vez desde el inicio de la crisis este año el empleo va a crecer el uno coma seis por ciento y el que viene el uno coma siete por ciento

suficiente y vamos a seguir concentrados en la tarea hasta recuperar el empleo previo a la crisis nunca hemos sido autocomplacientes pero tampoco admitimos visiones catastrofistas ustedes han tenido y tienen responsabilidades de gobierno

que aconsejarían también un poco más de prudencia y de humildad a la hora de plantear esta cuestión de esta manera como se plantea y le recuerdo que el objetivo del cinco por ciento en intermediación laboral está marcado por esta cámara por esta cámara y no hemos renunciado aunque somos realistas

para conseguirlo solo le digo que entre dos mil trece y dos mil catorce hemos incrementado la tasa de intermediación en un diecinueve coma dos por ciento

que trabajan con lanbide cuando dos años antes eran

empresas hoy somos la tercera comunidad del estado en intermediación laboral y nuestro objetivo es ser la primera

reorganización y el acuerdo interno alcanzado en lanbide estoy seguro de que nos ayudaran a lograr este objetivo eskerrik asko eskerrik asko

no somos la primera comunidad en esta materia no somos pioneros porque hay otras comunidades que usted sabe muy bien como reconoció el señor alustiza en la comisión de empleo y asuntos sociales

no y la primera no pese a la ingente cantidad de recursos públicos

y para que luego el consejero en una reciente comparecencia en este parlamento nos diga y se quede tan ancho que las empresas pasan de lanbide porque hay que tener cuajo

esta afirmación con las cifras que le estoy dando sí sí dijo que las empresas pasan de lanbide ya que usted hace una referencia a los mandatos de esta cámara

aprobados a propuesta del partido popular fue que la oferta

a la demanda de trabajadores y nada de nada nada de nada me puede decir usted hoy aquí en esta tribuna qué están haciendo

a la demanda existente porque con estas cifras y diciendo que las empresas pasan de lanbide entiendo que ustedes parecen poco más o menos que han tirado la toalla por lo tanto señor lehendakari qué credibilidad puede tener un gobierno que incumple sus promesas en una materia en una de las principales materias en una de las materias esenciales como es el el desempleo que parecen muchos ciudadanos vascos es que esa es la principal preocupación de los ciudadanos vascos esa es la que aparece todos los días en las encuestas y mire compromiso adquirido no solo por el mandato de esta cámara sí en una resolución en el plan estratégico de lanbide sino también porque el propio señor alustiza decía en esa comisión es que era director de lanbide ahora no es director de lanbide pero bueno es director de lanbide es verdad que los partidos

y que sea incapaz de cumplir sus compromisos dos coma uno por ciento al principio de la legislatura dos coma seis

que son incapaces de cumplir y encima nos dicen que las empresas pasan de lanbide

luego viene usted aquí y nos dice que para este gobierno lo importante son las personas mire señor lehendakari cada vez que hace usted esta afirmación y luego viene

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora garrido si todos los temas que lleva usted los prepara como ha preparado esta segunda intervención después de la primera

al objetivo de ser la primera o a la constatación o a la afirmación que yo supuestamente hubiera hecho de que somos la primera comunidad cuando he dicho que somos la tercera comunidad no me ha escuchado usted y le he dicho que no somos autocomplacientes que tenemos mucho por hacer que hemos conseguido superar la barrera de las cinco mil empresas que trabajan para lanbide o que trabajan con lanbide cuando dos años antes eran menos de cuatro mil empresas insisto en que

lograrlo yo tengo como objetivos una mayor orientación a la empresa en estos momentos estamos sí concentrados en la persona desempleada pero es necesario dar un paso más y conseguir un conocimiento exhaustivo de las empresas tengo como objetivo también el contacto estrecho con las empresas

adoptando un modelo más colaborativo y participativo tengo como objetivo también un modelo de concertación

pero no mire usted siempre a un lado pueden hacer ustedes también mucho más para mejorar la intermediación laboral le voy a citar tres iniciativas que contribuirían a mejorar este ratio una derogar las reformas laborales del gobierno español muy especialmente la última de dos mil catorce dos cumplir

tanto las activas como también las pasivas esto significa cumplir el estatuto que es ley orgánica que el gobierno español de su partido está incumpliendo y tres detener la agresión constante del gobierno español a las capacidades reconocidas

de ejecución de políticas activas de empleo que ha obligado a este gobierno a interponer recursos de conflicto competencial le invito

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari señor portavoz del gobierno vasco

pinosolo no está cerrado sigue vivo y tiene que aclararse recordemos que se puso en marcha en el ayuntamiento de leioa una comisión de investigación que emitió unas conclusiones contundentes y denunció graves irregularidades mala gestión derroche de dinero público información privilegiada clientelismo y responsabilidades políticas y digo políticas en la figura del señor

el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco recoloca en un momento determinado a este señor en metro bilbao como director gerente a partir de ahí

la última en concreto lo que propone es pedir al gobierno su destitución en último momento se llega a un acuerdo político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi esa petición y salvar al gobierno pero se decide remitir este asunto a la comisión de ética del gobierno vasco a pesar de que ambos grupos sabían que esa comisión no tenía competencia y efectivamente así lo dice esa comisión en su dictamen no es competente para analizar estos hechos a la vista de todo esto le pregunto si el gobierno seguirá defendiendo el mantenimiento en su cargo del señor

dos meses tuve ocasión de pronunciarme sobre esta cuestión a propósito de la consulta que se formuló a la comisión ética que tengo el honor de presidir constatábamos efectivamente que la persona a la que usted se refiere no es un alto cargo de este gobierno es un director de una sociedad pública que depende de un consorcio uno de cuyos miembros es el gobierno vasco y por tanto es una persona que no está incluida en el ámbito de aplicación de la ley uno barra dos mil catorce de este mismo parlamento la que

las condiciones del buen gobierno como consecuencia de esto esa persona tampoco está incorporada al catálogo de altos cargos que el gobierno tiene que publicar periódicamente y en consecuencia

habilitados con carácter universal para emitir juicios éticos en relación con todas las personas que desempeñan funciones públicas en todas las administraciones no nos pronunciamos en relación con esta persona como tampoco nos pronunciamos en relación

con altos cargos cuya actuación pueda ser objeto de acusación o de denuncia por parte de la oposición

cuando en el caso al que usted se refiere ha habido una investigación judicial que como seguro que no se le oculta ha concluido recientemente con un acuerdo de archivo a partir del momento en el que la fiscalía decide archivar un expediente pues razón especial para que la administración pública no preste especial atención a una

pero tampoco es competencia de este consejero emitir juicios éticos con carácter universal sobre todos los altos cargos de todas las administraciones públicas por eso supongo que

ni con respecto a este caso ni con respecto a ningún otro eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

señor erkoreka si ustedes sabían perfectamente que esta comisión ética no es competente por qué acuerdan una transaccional con el grupo socialista para llevar este asunto a la comisión ética
por qué lo hacen para ganar tiempo para disimular

nosotros la próxima semana vamos a plantear una iniciativa para que este parlamento pida su destitución porque consideramos que las responsabilidades políticas siguen estando

en relación a esta cuestión de manera contundente en relación al escrito de la fiscal por el que archiva el caso consideramos que es

un alegato de la defensa que un intento de arrancar un proceso que busque la verdad el motivo principal por el cual archiva pinosolo es por prescripción

ni plazos y en nuestra opinión hay que seguir investigando hay que seguir denunciando este asunto políticamente y judicialmente hay que seguir

lo que está claro es que lo que no ha prescrito son las responsabilidades políticas perfectamente señaladas en la comisión de investigación del ayuntamiento de leioa eso no ha prescrito y tampoco ha prescrito la mala gestión en el ayuntamiento de leioa y tampoco ha prescrito su negativa

a responder a los grupos parlamentarios en este parlamento y tampoco la recolocación de esta persona en una entidad como la de metro bilbao todo esto no ha prescrito y por lo tanto vamos a seguir defendiendo

gobierno los miembros del gobierno representados en el consejo de administración exigiendo su destitución las responsabilidades políticas están perfectamente probadas es un absoluto escándalo y evidentemente nos reservamos

nuevas actuaciones judiciales para que se conozca la verdad hay camino se puede hacer y nosotros vamos a estudiar ese camino responsabilidades políticas perfectamente demostradas

en el futuro y eso es lo que queremos seguir haciendo eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

me sorprende sobremanera señor maneiro que una persona tan apegada habitualmente a la adjudicatura y a la fiscalía que apela sistemáticamente a las mismas reivindica sus pronunciamientos cuando le favorecen y que encima expresa su propósito sistemáticamente de hacer uso de ellos fíjese ayer se marcaba el objetivo de que acabaran imputados todos los consejeros del gobierno vasco alguien tan apegado

resulta que desautoriza abiertamente una resolución de la fiscalía

un decreto de la fiscalía de bizkaia dictado después de ocho meses de investigación

que acuerda formalmente archivar las diligencias de investigación y usted dice no no hay que investigar mucho más supongo que aceptará

ese decreto de la fiscalía está pronunciado en derecho con el derecho vigente ese que usted invoca permanentemente y exige su aplicación y supongo que respetará esa resolución aunque no sea de su gusto quiero suponer con respecto a las responsabilidades políticas que dice usted que todavía subsisten mire lo mejor que puede hacer es presentarse

obtener una posición en el pleno del ayuntamiento

pero por favor no insista una y mil veces

un acuerdo tan evidente tan claro de la fiscalía de bizkaia después de una investigación de muchos meses

se resuelve como se resuelve no la desautorice tan claramente solo por el hecho de que no sea de su gusto hombre no enjuiciemos las resoluciones judiciales en función de los intereses políticos

ez dogu francking a behar ez dogulako nahi francking a

me ha parecido entender que el gobierno está haciendo fracking parece que lo hacemos un día sí y otro no y no es cierto no existe

en euskadi y una vez que hemos aclarado que el gobierno va a defender el marco competencial y la soberanía del parlamento vasco para poner en marcha y para aprobar leyes de vista práctico y jurídico sí me gustaría analizar el impacto que tiene esta normativa porque eso es lo que estamos haciendo en este momento sobre los permisos que tiene

que por cierto no está haciendo fracking insisto sino que simplemente está analizando y está realizando un estudio de impacto ambiental que está siendo revisado

la nueva ley hay que señalar además que no existe legislación ni en el estado ni en europa que prohíba la explotación

que establecieron que la decisión de explorar el gas no convencional explorar investigar corresponde a cada uno de los estados de la unión y que se puede dar respuesta a las preocupaciones

de otras normativas más estrictas dependiendo de lo que cada uno diga y que además el veintidós de enero de dos mil catorce recientemente realiza una serie de recomendaciones relativas a unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos utilizando la fracturación hidráulica lo dice una serie de principios mínimos que ya se superan

en estos momentos en el estudio de impacto ambiental cuando se ha aprobado la ley en parlamento en cuanto a la ley aprobada y entrando a algunos de los artículos que se han modificado el artículo tres modifica el artículo veintiocho de la ley dos barra dos mil seis de suelo y urbanismo y dice que en terrenos clasificados como suelo no urbanizable en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos

sobre las características geológicas ambientales paisajísticas o socio económicas de la zona o en relación con otros ámbitos competenciales de la comunidad autónoma en función de lo que establezcan los instrumentos de ordenación territorial urbanística y ambiental textualmente y limita la explotación a la inexistencia de efectos ambientales negativos pero tales efectos negativos deben ser determinados y evaluados mediante resolución administrativa del órgano sustantivo en el curso de procedimiento de evaluación de impacto ambiental que es lo que estamos elaborando

lo que tenemos que hacer es elaborar el estudio de impacto ambiental y que el órgano correspondiente analice si realmente existe este impacto o no previamente no existe dicha resolución por tanto entendemos que tenemos que atender lo que dice esta ley y analizarlo concretamente en lo referente al artículo cuarto de la ley seis barra dos mil quince dice

debe estar debe contar con una evaluación medioambiental estratégica a día de hoy solamente tenemos la estrategia ya aprobada y como usted bien sabe lo he dicho en más de una ocasión estamos revisando la estrategia energética

es cuando tendrá que tener su correspondiente estrategia evaluación medioambiental estratégica no antes

es en la nueva donde tiene que existir esto no puede ser de otra manera las actuaciones que se han contemplado hasta el momento el análisis que se está evaluando desde shesa no es ni un plan ni una estrategia la estrategia es insisto la estrategia energética en el artículo quinto se añade un nuevo párrafo al artículo veintinueve punto uno de la ley uno barra dos mil seis de la ley de aguas

a ella y habla del riesgo de vulnerabilidad media alta o muy alta bueno pero no hace referencia a aquellos lugares de vulnerabilidad baja muy baja o no apreciable por tanto habrá que analizarlo también

a analizar qué es lo que está ocurriendo en esa evaluación de impacto ambiental habrá que considerarla

en el artículo sexto dice que las autoridades y funcionarios públicos de la administración de la comunidad autónoma del país vasco velarán por el respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley

las medidas oportunas para la paralización de las actividades que se realizaran contraviniendo lo dispuesto en ella así como la reposición de la situación alterada a su estado originario textualmente insisto

por tanto establece la paralización de cualquier actividad que contravenga la ley pero es que no hay ninguna actividad que contraviene la ley ni hay ninguna necesidad de reponer ninguna situación alterada puesto que no se ha alterado nada por tanto en lo que lleva trabajando el gobierno de la comunidad autónoma de euskadi en este tema no se ha constatado ninguna actuación contraria a la ley aprobada ni a las anteriores ni a esta en este caso ni se ha actuado

trabajar en ninguna reposición por tanto a pesar del complejo escenario jurídico que se ha dibujado ahora con la iniciativa que ha puesto en marcha

debemos afrontar la comisión bilateral como le decía en la que reitero nuestra voluntad de defender la ley y estamos puntualmente analizando todos y cada uno de los artículos de la ley aprobada y analizando cómo afectan a los permisos que tenemos en este momento en vigor nada contra la ley sino todo lo contrario cumpliendo estrictamente lo que figura en ella eskerrik asko

legebiltzarburu anderea una vez más siguen jugando con las palabras

pero usted no dice toda la verdad cuando dice que no están haciendo fracking el gobierno vasco por medio de una empresa cien por ciento pública

pedidos varios permisos de investigación para recursos no convencionales

en estos momentos y en esos permisos además se apunta se apunta cuál va a ser la técnica que se va a utilizar tanto la exploración porque en la exploración también se hacen sondeos y se utiliza la técnica

porque nos quieren decir ustedes que están pidiendo permisos de investigación para recursos no convencionales sin la intención de explotar

un permiso de investigación se pide y lo dice la ley del sector de hidrocarburos

la investigación los permisos de investigación se tiene para obtener permisos de explotación

con empresas norteamericanas para la explotación del fracking o me quiere decir que petrichor y cambria dos empresas norteamericanas

para ayudarnos a saber cuáles son los recursos energéticos que tenemos en nuestros subsuelos no y así están los convenios existen repartos porcentuales

de cuando se dé la explotación cómo se va a repartir los beneficios de esa explotación porque es lógico por eso han firmado esos contratos por lo tanto cuando hablamos de fracking

que se piden para posteriormente hacer explotación y rentabilizar esos recursos energéticos para eso se piden y de eso estamos hablando del fracking ya vale

ustedes han puesto dinero público para poner en marcha toda la maquinaria del fracking en la comunidad autónoma vasca

y esta cámara les ha dicho que no que ese no es el camino que eso es una estrategia energética errónea seguir por los combustibles fósiles y más aún

por lo tanto cuando hablamos de fracking claro que ustedes han puesto dinero público y la maquinaria para hacer

y hablamos de una ley que se ha aprobado por esta cámara y ustedes parece ser que todo lo fían a las evaluaciones de impacto ambiental pero yo leo el artículo tres

del fracking cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas ambientales paisajísticas o socioeconómicas

que la fractura hidráulica tiene consecuencias negativas una evaluación de impacto ambiental no dice

tiene o no no no no no dice es una evaluación de impacto ambiental dice si son asumibles

si son asumibles esos efectos

efectos medioambientales negativos lo sabemos perfectamente hasta qué punto son asumibles nos lo podrá decir una declaración de impacto ambiental o toda una evaluación de impacto ambiental por lo tanto no quieran

a declaraciones de impacto ambiental hechas ad hoc no el artículo tres dice clarísimamente qué es lo que está prohibido en la comunidad autónoma vasca pero es que además lo más lógico

parar todos los permisos dejar de tramitar esos permisos que parece ser que siguen ustedes tramitando parar

que son obligatorias en esos permisos de investigación pararlas y hacer una evaluación estratégica de toda la planificación energética incluida la posible explotación

sin una evaluación estratégica y no lo están haciendo ustedes en estos momentos lo más lógico y lo que le recomendamos y sobre todo le pedimos desde euskal herria bildu es que

todos los permisos y hagan una evaluación ambiental estratégica con la participación social que es necesaria y la política también desde luego para saber

si es necesario tirar por el camino de la explotación de los recursos no convencionales la comunidad autónoma vasca eskerrik asko maeztu jauna

eskerrik asko presidente andrea señor maeztu yo no juego con las palabras

desde que ha subido aquí lo que está haciendo es mezclar no hacemos fracking hacer fracking como usted bien sabe es una técnica muy determinada por la cual uno hace un sondeo introduce unos determinados

introduce unos determinados elementos químicos o no o lo hace a través de otra técnica y analiza qué es lo que está ocurriendo eso es hacer fracking

en un determinado lugar usted está confundiendo los términos no yo el estudio de impacto ambiental lo estamos haciendo para saber

como usted bien dice qué consecuencias medioambientales tiene que para eso sirve porque toda actividad que realizamos los humanos toda tiene impacto ambiental

algunos más asumibles con medidas correctoras y otros inasumibles como usted bien sabe pero toda actividad la tiene por tanto no me confunda tampoco en esos sentidos y a priori es difícil saber usted debe haber estudiado mucho más que yo no lo dudo y sabe a priori que eso tiene unas consecuencias negativas

he leído un poco y desde luego no soy experta en la técnica del fracking lo que vamos a hacer es analizarlo y saber realmente

sino económicamente y socialmente las tres patas de la asunción en estos momentos de la sostenibilidad pero para eso

tampoco analizando y haciendo un estudio serio es lo que pretendemos hacer

usted dice que saber analizar nos da el derecho

el derecho no la obligación dos cosas diferentes dos palabras diferentes también derecho a saber si una vez

analizada la sostenibilidad si eso es posible y se toma la decisión y se tomara

mucho más adelante entonces tendríamos el derecho que no quiere decir que lo vayamos a ejercer ni que lo fuéramos a ejercer en el hipotético caso de que llegáramos hasta allí

se hizo una venta por cierto no por este gobierno se hizo una venta

que tenemos nosotros por supuesto que sí en cualquier caso permítanos que hagamos el análisis serio y debatamos sobre lo que analicemos déjanos hacer el análisis cumpliendo estrictamente la ley que ustedes han aprobado y digo ustedes porque yo no tengo voto en esta cámara el treinta de este año vamos a analizarlo y vamos a verlo pero no hagamos apriorismos y no me hable de la evaluación ambiental estratégica de la anterior ley por cierto

tiene su evaluación de impacto ambiental no la estratégica que usted solicita y le he dicho que en estos momentos estamos haciendo la revisión de esa estrategia energética

tiene esa estrategia de nuevo los pilares que tiene la anterior las energías renovables y la eficiencia energética y como tercera pata porque es que de la situación que tenemos ahora a la de la cien por ciento

hay que hacer un tránsito utilizando el gas y no hablamos de nada más que utilizando el gas como elemento de tránsito de elemento fósil del petróleo

que diga la ley que tiene que llevar no nos vamos a escapar no se preocupe lo vamos a cumplir estrictamente eskerrik asko eskerrik asko tapia

presidenta buenos días de nuevo lo cierto es que en los últimos días en las últimas semanas estamos escuchando a diferentes

de distintos partidos políticos lanzar duras críticas

y al cálculo del cupo esto no es nuevo esto se viene produciendo desde hace algunos años y de vez en cuando

nuevas declaraciones como digo de distintos dirigentes políticos que vienen a decir que el cupo vasco está mal calculado y que el sistema de concierto económico

del cupo supone una sobrefinanciación para los ciudadanos vascos y por lo tanto es motivo de crítica por todos estos dirigentes políticos de distintos partidos

lo hemos escuchado recientemente en boca del señor pedro sánchez máximo responsable del partido socialista se lo hemos escuchado

se lo hemos escuchado a la presidenta de andalucía susana díaz se lo hemos escuchado al máximo responsable de los socialistas catalanes el señor iceta

al anterior presidente de la comunidad de madrid ignacio gonzález

al consejero de hacienda de la comunidad de madrid diferentes comunidades autónomas han venido planteando esta cuestión también en los últimos días lanzado duras críticas hacia el sistema de concierto

dirigentes en los últimos años incluso representantes del partido popular y del partido socialista

de distintas mociones e iniciativas parlamentarias presentadas por upyd en distintas instituciones en diferentes ayuntamientos españoles en diferentes comunidades autónomas y esto lo que evidencia es que

de concierto económico y el cálculo del cupo pues evidentemente provoca enfrentamientos entre ciudadanos provoca conflictos

provoca desconfianza y en última instancia provoca desigualdad entre ciudadanos que pertenecen al mismo país técnicos en la materia

últimas semanas pero también en los últimos meses y en los últimos años intelectuales como ruiz soroa como joseba arregi el propio señor lópez

que asesora al partido socialista en la reforma constitucional ha venido a decir también incluso en sede parlamentaria en la comisión correspondiente y a través de los escritos que ha publicado en prensa durante los últimos años que efectivamente

del cupo supone una sobre financiación para los ciudadanos vascos llama la atención en primer lugar la incoherencia y la hipocresía política del partido popular y del partido socialista obrero español es ciertamente vergonzoso el partido popular

critican el sistema de concierto económico y el cálculo del cupo al menos militantes y dirigentes destacados de esos partidos políticos mientras que en euskadi

incoherencia e hipocresía política porque en fin todas las ideas democráticas pueden defenderse pueden argumentarse pero lo que al menos debemos pedir a los partidos políticos a todos los partidos políticos es que sean coherentes que defiendan las mismas cosas en euskadi que fuera de euskadi por simple coherencia política por honestidad intelectual y lo cierto es que a día de hoy como todos ustedes saben solamente hay un partido político que se llama upyd

en todos los lugares yo desde el año dos mil nueve llevo criticando este sistema de concierto económico y el cálculo del cupo lo he hecho en sede parlamentaria

hacerlo así pero yo tengo una máxima que consiste en decir aquello que pienso y en denunciar todo aquello que me parece injusto a pesar de que

en euskadi que fuera de euskadi no así otros partidos políticos hay quien dice

sin embargo dentro de un estado aquellos derechos que solo pueden disfrutarlos algunos ciudadanos y no otros evidentemente no pueden ser considerados derechos

incluso también por parte de dirigentes del partido popular y del partido socialista de euskadi

obrero español que el sistema es constitucional el sistema es igualitario es positivo es bueno para la ciudadanía si es tan positivo si es tan bueno si es tan igualitario si efectivamente no rompe la solidaridad

dentro del país del que somos ciudadanos si son todo cosas positivas por qué se le niega a cataluña un concierto económico

inviable porque no es posible porque no es asumible y ahí también se pone de manifiesto una incoherencia flagrante del partido popular y del partido socialista obrero español se dice y dicen que el sistema es igualitario que el sistema es bueno etcétera sin embargo

a cataluña y se lo niegan por cierto con razón porque ya digo que en ese caso el sistema sería insostenible hay argumentos

explican perfectamente en qué se basa esta desigualdad que nosotros venimos denunciando y desde luego es evidente que

y a veces cuesta entenderlo pero si se lee y uno se informa evidentemente hay argumentos técnicos que lo explican perfectamente en primer lugar cabe decir que es un sistema que únicamente se aplica a una parte de la ciudadanía española y no a los demás ciudadanos con lo cual esto ya es una excepción en sí mismo y por lo tanto supone una ruptura de la desigualdad pero los argumentos técnicos creo que son suficientemente claros

interregional a través del que el estado aporta recursos a las comunidades de menor renta para que estas puedan prestar servicios similares a los de territorios más ricos por otro lado la valoración del resto de las competencias estatales no transferidas a euskadi está claramente sesgada a la baja y en tercer lugar el ajuste técnico que se realiza para conseguir que cada administración se quede con la parte del iva que en última instancia soportan sus ciudadanos también está sesgado

necesarios para realizar el ajuste se hacen utilizando valores de los coeficientes que recogen el peso de estas comunidades

y en la base del impuesto que no coinciden con los reales estos son los argumentos técnicos pero los argumentos políticos son evidentes es un sistema que únicamente disfrutan algunos ciudadanos mientras que otros ciudadanos no pueden disfrutar de ese sistema

quebraría el estado desaparecería la solidaridad entre los ciudadanos de un mismo país que haya partidos políticos conservadores

que defiendan determinados privilegios entra dentro de la lógica que partidos políticos que se llamen progresistas efectivamente defiendan también este tipo de sistemas

no nos entra en la cabeza nosotros seguimos defendiendo los mismos principios que hemos venido defendiendo siempre aquí y en cualquier lugar solidaridad igualdad

etcétera esto es lo que reivindicamos pero en todo caso señor lehendakari le pregunto hasta cuándo

y el gobierno vasco van a seguir oponiéndose a corregir o a derogar este anacrónico y oscurantista sistema gracias

hemen erabaki behar dugu nos tenemos que esforzar en mejorar las condiciones en la dependencia o nos tenemos que esforzar en alcanzar la plena soberanía

reconocemos al concierto económico como una herramienta útil hacia otro nuevo marco jurídico político porque si el autogobierno es bueno según el discurso que mantiene el partido nacionalista vasco aún reconociendo como lo reconoció el señor erkoreka que nos deja sin la mitad de recursos que nos deja sin la mitad de recursos cómo sería poder contar con todos nuestros recursos

ese es el debate a criterio de euskal herria bildu que debemos trasladarle a la ciudadanía vasca kontzertuaren aurkako eraso betean

se ha vuelto a reavivar el interés por el cupo y el concierto y ha resurgido para reivindicar nuestro sistema singular de relación financiera con el conjunto de españa

en el lugar que le corresponde la mayoría de la mesa ha considerado que no era urgente algo tremendamente sorprendente los mismos partidos

ante una polémica sin bases sobre el concierto y el cupo quienes han proclamado con más alarmismo y aparato que estamos en un momento gravísimo de ataque a nuestro autogobierno son los que han propuesto y aprobado posponer cualquier declaración inequívoca de este parlamento vasco

vaya por delante la firme defensa de los socialistas vascos del concierto y de su significado de acuerdo bilateral que hace compatible la singularidad con la solidaridad y quiero subrayar el compromiso explícito del psoe con el sistema de concierto

en su reunión de julio así está explicitado públicamente y así se ha ratificado en estos días es verdad que ha habido voces socialistas

se han equivocado radicalmente al hablar del cupo pero una vez que la respuesta inequívoca de los máximos responsables del partido en españa y en euskadi ha sido despejar y rechazar cualquier cuestionamiento sobraban forzados desgarramientos de vestiduras y agravios como los que han abundado aquí

lo que deberían preocuparnos de verdad son los problemas reales por ejemplo cómo arreglamos las diferencias sobre el cupo con la administración central los socialistas hemos preguntado aproximadamente una decena de veces al consejero de hacienda en esta legislatura sobre esta cuestión y no hemos obtenido

hay dos concreciones en una primera respuesta cuantificó las diferencias a finales del dos mil doce en ochocientos ocho millónes de euros y en su última respuesta lo cuantificó en mil ciento ochenta y cuatro millónes de euros y nada más bajo el mantra de la complejidad técnica

o los pasos que se van a dar para buscar un acuerdo con el gobierno central y podríamos compartir la posición del gobierno vasco de hecho el anterior ejecutivo

pero nos tenemos que quedar en el podríamos porque este gobierno no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo de explicación no ha fundamentado por qué la cifra de los desacuerdos se ha ido engordando hasta superar el diez por ciento de los presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi

para encauzar una posición conjunta sin embargo cuando las mismas complejidades técnicas en las que se refugia el consejero llevan a que responsables políticos de fuera de euskadi interpreten erróneamente nuestro sistema entonces sí entonces sí aparece este gobierno tan silencioso en lo otro para alzar la voz exageradamente

se presente ante los vascos como el único defensor de nuestro autogobierno y a nosotros nos han sobrado comentarios desenfocados y que entendemos incorrectos por eso hemos trasladado las aclaraciones pertinentes a quienes los han hecho y en cualquier foro que se nos han solicitado pero nos ha faltado

hemos echado en falta voluntad pedagógica y altura institucional está muy bien proclamar que el concierto y su derivación el cupo no es un privilegio compartimos esa idea pero hay que explicárselo a quienes lo ven así y argumentarlo no convertirlo simplemente

y aquí también nos ha faltado información la ley del cupo se ha venido acordando desde mil novecientos ochenta y uno con periodicidad quinquenal siempre ha habido dificultades siempre ha habido complejidades técnicas y de hecho la ley se ha actualizado en ocasiones incluso

se alcanzó el último acuerdo entre un gobierno socialista en españa y un tripartito nacionalista en euskadi

a pesar de todo incluso ahí se llegó a un acuerdo necesario y la novedad en esa última ley fue introducir la cláusula de prórroga automática y mucho nos tenemos que esa previsión se quiera convertir por algunos en una excusa renovar y renegociar la ley quinquenal y nosotros creemos que esa situación a quien más perjudica es a nosotros a los vascos no por una cuestión de cuantía

o debiéramos haber pagado algo menos porque lo que hemos dicho a los compañeros socialistas que han errado en sus comentarios nos vale también para la ciudadanía vasca hay que aportar

soluciona los problemas de financiación de otras comunidades ni pagar menos puede eximirnos de ejercer nuestra responsabilidad fiscal y de luchar a fondo contra el fraude porque partimos del principio de que aunque los vascos pagásemos el doble de lo que ahora pagamos en el cupo eso no iba a solucionar los problemas de financiación que otras comunidades autónomas tienen

es la diferencia en presión fiscal que seguimos manteniendo con europa más de cinco puntos eso sí solucionaría

las diferencias y los problemas de financiación de otras comunidades no es euskadi la que puede solucionar ni con más ni con menos los problemas de financiación de otros territorios pero el desacuerdo que se arrastra nos perjudica por una cuestión contable porque en los presupuestos se acaban fijando cantidades que luego no existen realmente

y nos perjudica porque no aclarar las diferencias no sentarse en una mesa alienta las sospechas de quienes no entienden nuestro sistema de financiación o los que directamente quieren que desaparezca como hemos oído en esta cámara por cierto

a todos a los socialistas seguro pero a ustedes también porque es cierto que este gobierno de españa a punto de hacer las maletas ha sido sordo

lo que es una mesa de verdad de negociación para dialogar con nadie pero es igual de cierto que el gobierno vasco también tiene su propia responsabilidad porque si son verdad

los cupos pendientes desde el dos mil siete y cuál es la nueva metodología que se va a plantear para actualizarlo en el quinquenio dos mil once dos mil dieciséis

y si fuera verdad que estamos ante campañas orquestadas contra el autogobierno

lo oportuno sería compartir esa posición con el resto de los grupos de este parlamento y trabajar para que la defensa de los intereses de la comunidad autónoma sea conjunta y yo quiero plantear aquí solemnemente que seamos capaces en este parlamento todos los partidos

planteemos una posición conjunta de defensa del concierto eso es lo que queríamos plantear

que la mayoría de la mesa estimó que no era urgente y por lo tanto que no se discutiera en este parlamento

que los socialistas hemos estado siempre en una actitud de colaboración en defensa de los intereses de euskadi hace ahora seis años

para dotar de mayor seguridad jurídica la capacidad normativa que reconoce el concierto no hacía falta era algo que se podía haber hecho aquí se podían haber traído los acuerdos fiscales de las juntas a ratificación del parlamento vasco y hubieron tenido rango de ley

que hicimos nuestra con el resto de la cámara y se modificó nada menos que la ley orgánica del poder judicial y la del tribunal constitucional para

y el congreso de los diputados con nuestro apoyo no por cierto con el del pp que votó en contra consiguió dotar de garantía jurídica a esas normas fiscales no se hizo aquí se podía haber hecho el pnv no quiso hacerlo era mucho más sencillo ratificar en el parlamento los acuerdos fiscales de las diputaciones y haberlas dotado de rango de ley como tienen en navarra no se quiso hacer

se aprobó y se ratificó por parte de la mayoría de los grupos políticos de la cámara del pnv del partido socialista y de otros grupo menos el partido popular esa es la historia reciente de nuestro concierto la de los grandes acuerdos y la realidad de la reciente historia sobre el cupo

la de las reiteradas discrepancias de modo que si no queremos que los que están interesados en cuestionar permanentemente nuestro sistema se carguen de argumentos

las mayores explicaciones posibles y se hiciera una campaña de pedagogía que creo que es muy necesaria para que el conjunto del estado entienda que esto no es un privilegio

que deriva de la elaboración de la propia constitución española eskerrik asko pastor jauna egibar jauna zurea da hitza

baina gobernuak berak igorri duen txosten batean en el documento que se ha remitido a la ponencia

del autogobierno y específicamente también se habla del concierto económico

y se aludió también aquí pues que el año base el último que tenemos acordado

la necesidad de volver a aprobar una ley quinquenal

son indisociables a los efectos sí en ese informe subraya la necesidad de introducir ese carácter evolutivo respetar ese carácter evolutivo que tiene el concierto económico y se habla en ese informe

lo mismo que el dos mil catorce se modifica la ley del doce cuando se entra a contemplar nuevas figuras tributarias y se incorpora ya en lo que es el engarce del concierto económico se habla del progreso normativo pero

deja visibles algunos signos de fragilidad el concierto económico en lo que se refiere a qué

carece del mecanismo que garantice que el estado negociará ese carácter evolutivo del concierto económico ese mecanismo que vincule también al estado a tener que sentarse claro la bilateralidad tiene sus ventajas

y en definitiva si una de las dos partes no quiere sentarse

esa circunstancia que se advierte en ese informe así como otras circunstancias que afectan a ese intento

según dos sentencias que han salido con respecto al convenio de navarra todo eso también tiene que ser contemplado en la defensa del concierto que vayamos a hacer

aritzea mi objetivo hoy precisamente es poner esta primera intervención al servicio de la defensa del concierto económico y el cupo un objetivo que con la excepción de upyd compartimos todos los partidos políticos todos los grupos parlamentarios aquí presentes representados en esta cámara o representando a los partidos políticos vascos en esta cámara usted señor maneiro habla

falta de principios o pasmosa incoherencia en relación a otras formaciones políticas

a los demás usted y su partido en todo caso lo que plantean lisa y llanamente es la desaparición del concierto económico vasco y esta es su propuesta para euskadi ustedes han denostado el concierto económico sin pudor lo han calificado como derecho de pernada como privilegio impropio del siglo veintiuno ahora bien lo que usted nunca dice con claridad es cuál va a ser

de lo que usted plantea la ciudadanía vasca tiene que saber que la propuesta de upyd va en contra de su propio bienestar y calidad de vida lo tiene que saber no sé si su propuesta será mejor para españa y el resto

tengo mis dudas lo único seguro es que será peor para euskadi y la ciudadanía vasca y eso lo sabe usted señor maneiro y reconózcalo con claridad

usted dice que el desacuerdo en relación al cupo perjudica a los vascos además de haber también

que alimenta el conflicto que alienta a quienes no entienden el sistema propio de financiación

que se trata de un privilegio de acuerdo de acuerdo señor pastor pero me tendrá que reconocer que en la andadura

a pesar de las palabras de su secretario general actual no ayudan declaraciones como por ejemplo la siguiente el concierto económico es injusto insolidario y de derechas fin de la cita y cuando uno escucha esto de boca del presidente del partido socialista de euskadi señor eguiguren

hace diez años y los vaivenes que desde entonces se han dado también en lo que ha sido la participación de representantes del partido socialista de euskadi obrero español en el congreso de los diputados en votaciones

que se han venido manifestando o planteando en estos diez años uno entiende las declaraciones de los dirigentes del partido socialista en valencia en andalucía en cataluña

este mismo miércoles días después de lo que ha sido la declaración de su secretario general del partido socialista obrero español yo pido por tanto que traten

incidir en sus compañeros de partido y representantes institucionales en representación del partido socialista y creo que creo sinceramente que ustedes desean evitar el conflicto y en eso les animo

posible denik en todo caso yo les doy la bienvenida en relación a lo que es el espíritu de defensa del concierto por el que usted

antes les hemos dado la bienvenida también a otros planteamientos que han hecho en relación a lo que otros durante muchos años venimos defendiendo

aurrera egiten jarraitu egin ahal izateko o creo que el informe era enviado entre el conjunto de informes remitido por el gobierno vasco a la ponencia de autogobierno es

del modelo de concierto económico y el sistema de cálculo del cupo lo que es el concierto económico los principios del concierto económico la solidaridad del sistema del concierto y el concepto y metodología del cupo las cargas no asumidas e índice de imputación los ajustes y compensaciones el cupo liquido y ajustes en la imposición indirecta así como también los aspectos financieros del sistema

intervención a pesar de que no me esté escuchando en todo caso el sistema de concierto económico ha sido y es sobre todo un ejercicio de responsabilidad un ejercicio de responsabilidad compartida por todas las instituciones públicas

tanto en épocas de bonanza como de crisis económica en el ejercicio del sistema del concierto lo que hemos hecho siempre ha sido gastar con arreglo a lo que nos podíamos permitir ni más ni menos siempre hemos sido conscientes de que no podíamos pedir dinero al estado y que éramos responsables de todas nuestras decisiones de gasto y este es

que nos hemos dado y que hemos asumido nuestro modelo de siempre

creo que compartiremos todas y todos la sensación de que durante los denominados años de vacas gordas en otros lugares adoptaron decisiones de gasto muy por encima de las disponibilidades reales e incluso

en todo caso en euskadi gracias a la responsabilidad compartida no hemos conocido esta cultura del gasto estas inversiones por encima de nuestra capacidad financiera aquí todas las instituciones hemos pagado religiosamente lo que gastábamos y además

a través del cupo el cupo y de lo que es la negociación con el gobierno español en relación a lo que es la interpelación del señor pastor también le diría que

ustedes saben por las explicaciones que hemos venido dando que la metodología de determinación del cupo para el quinquenio

fue acordada en la comisión mixta del concierto económico el treinta de julio de dos mil siete por lo tanto el partido socialista

y aprobada por ley veintinueve barra dos mil siete de veinticinco de octubre

pero para este nuevo quinquenio se introdujeron algunas modificaciones en el contenido de la ley con el fin de adaptar la metodología del cálculo del cupo

durante el nuevo quinquenio en aquellos aspectos que planteaban dificultades

entre la administración del estado y la comunidad autónoma de euskadi cabe señalar además señor pastor que los presupuestos generales del estado de ese año dos mil siete año sobre el que se realiza la determinación del cupo del año para el quinquenio se incluían en los gastos

las llamadas cargas asumidas por la comunidad autónoma de euskadi y por otra parte que en los ingresos por tributos concertados de ese año en los presupuestos estatales

de tributos a las comunidades de régimen común vigentes en aquel año ese año dos mil siete

la revisión de la metodología del cupo y la revisión del régimen de financiación común del resto de las comunidades autónomas no obstante sí se conocía que el régimen de financiación común iba a ser reformado y que ello iba a conllevar un cambio importante

lo que supone un elemento básico a la hora del cálculo de las liquidaciones anuales del cupo por lo que se fijaron unas pautas de actuación para cuando ello se produjese

en el lado de los gastos al desaparecer las mencionadas dotaciones económicas e integrarse las mismas en el sistema de financiación y por otro en los ingresos al reflejarse los nuevos y mayores porcentajes de cesión de tributos en favor de las comunidades autónomas cabe indicar también que tras la reforma del régimen de financiación común indicado

las previsiones y pautas de actuación pactadas en la ley de cupo lo que supone que ambas administraciones mantenemos notables discrepancias que datan de legislaturas anteriores desde el año dos mil nueve en adelante desde el año en el que gobernaban el partido socialista obrero español en el conjunto del estado como el partido socialista de euskadi aquí en la comunidad autónoma

bien no quiero extenderme en lo que es la metodología del cupo y lo que son las discrepancias existentes en ese sentido estamos trabajando también con el gobierno español vigente durante esta legislatura en todo caso lo que defendemos por lo tanto es el concierto económico como un pacto bilateral y un componente esencial del gobierno vasco y defendemos también

eficaz y solidario esta es precisamente la filosofía del concierto económico y esta es nuestra responsabilidad compartida esta es la cultura de la gestión responsable de los recursos públicos

y para ello no es necesario atacar el concierto económico herriari begira sei ideia garrantzitsu zabaltzea dagokigula uste dut bat

presidenta vaya por delante que nosotros no atacamos nada nosotros no atacamos al concierto económico no utilizamos ese tipo de términos nosotros lo que hacemos es plantear argumentos

lo que tiene que hacer el resto de partidos políticos es presentar sus argumentos de tal forma que sean argumentos entendibles por el conjunto y ciertamente los argumentos tanto técnicos como políticos que yo he expresado en mi primera intervención pues efectivamente no han sido contrariados ni

por ninguno de los portavoces ni tampoco por el lehendakari que han defendido el concierto económico esto es exactamente así no han sido desmontados sino todo lo contrario

que algunos de los que han criticado recientemente el concierto económico y el cálculo del cupo han demostrado que efectivamente no conocen técnicamente el sistema

es evidente que no es una persona que se pueda decir que técnicamente conoce

pero todos sabemos de qué estamos hablando y por otro lado hay efectivamente técnicos en la materia que han explicado perfectamente bien que este sistema no es en absoluto solidario señor lehendakari en absoluto es

libros artículos escritos por personas muy solventes este no se lo voy a regalar porque no tengo otro pero aquí por ejemplo se presentan argumentos de peso

hablaba de que es un sistema privilegiado de obtención de recursos financieros lópez basaguren joseba arregi ruiz soroa y tantos otros

personas que saben de qué va el tema dicho esto dicho que efectivamente hay personas que critican el concierto económico sin conocerlo también es cierto que

los que defienden el concierto económico mienten como cosacos señor lehendakari usted dice que es un sistema solidario es más dice que

de lo que nos corresponde por lo tanto siguiendo ese argumentario la propuesta de upyd de suprimir el concierto económico sería bueno para los vascos

realidad por lo tanto algunos mienten para defender el concierto económico otros dicen la verdad hemos escuchado también a diferentes dirigentes socialistas y populares en los últimos tiempos decir claramente que es un sistema privilegiado al señor maroto

efectivamente hay muchos que ni siquiera disimulan en todo caso yo los argumentos técnicos que he planteado antes los mantengo y no han sido

no han sido rebatidos porque son rigurosamente ciertos y están perfectamente demostrados

aún más tanto en el marco español como en el marco europeo un sistema de estas características anacrónico y oscurantista efectivamente no tiene un pase va a cambiarse antes o después soluciones el federalismo el federalismo para el conjunto de españa esa es la

no uniformidad pero sí igualdad de derechos federalismo simétrico solidario solidaridad justicia claridad financiación igualitaria fin de los privilegios

y excepcionales esos son los principios en los que se basa nuestra propuesta repito lo que decía antes aquellos derechos que solo pueden disfrutarlos algunos ciudadanos mientras otros ciudadanos no pueden disfrutarlos

son privilegios por lo tanto esas son las soluciones y evidentemente la incorporación de euskadi y navarra a la hacienda común a través de la reforma constitucional pertinente y necesaria hay que defender por lo tanto

simétrico y solidario conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias que exista una hacienda común sin excepcionalidades anacrónicas defender la igualdad y la solidaridad

es buena es buena para todos para el conjunto de la sociedad porque la igualdad siempre es positiva y buena buena para los ciudadanos vascos
y buena para el conjunto de los ciudadanos españoles evidentemente presentaremos la correspondiente moción eskerrik asko maneiro jauna

tenía prisa el señor egibar por intervenir bien yo lo primero que quiero decir es que yo creo que ustedes se han precipitado un poco diciéndole ongi etorri a estos señores porque después de oírle no han pasado del felpudo

en la parte previa en la cáscara el resto siguen ustedes con el mismo viejo discurso de siempre
por lo tanto no aprecio yo demasiada evaluación pastor jauna interpelazioa da y tengo dudas de si será posible por ustedes

de acuerdo unánime o lo más mayoritario posible en defensa del concierto que reitero y reafirmo

en lo que nos corresponde a los socialistas vascos para que esto sea así y vuelvo a reiterar

que es necesario hacer pedagogía desde la institución en este caso que es del gobierno vasco nosotros en lo que nos toca

en aquellas federaciones del partido socialista que han hecho declaraciones que entiendo y entendemos radicalmente equivocadas y queremos reiterar también nuestra defensa unánime del concierto pero voy a discrepar con usted en esto de la tibieza o los vaivenes o las contradicciones

eso se demuestra con hechos y los dos momentos más importantes de defensa del concierto han sido dos

de las haciendas forales y ahí fuimos nosotros los que dimos el paso adelante y pusimos los votos necesarios para que se aprobase

y por otra parte el gran momento de peligro del concierto fue con la

de reconocer a las haciendas forales como una hacienda más dentro del estado español y nosotros fuimos los que defendimos a través de la abogada del estado con zapatero de presidente el derecho de las haciendas vascas a ser reconocidas como una hacienda más que fue lo que reconoció finalmente el tribunal de luxemburgo

las cuatro haciendas forales y la hacienda estatal pero aquello no se produjo por casualidad se produjo por una deficiente gestión que el pnv hizo del tema de las vacaciones fiscales en los que nosotros colaboramos porque sé que me va a decir el señor egibar en la réplica

miembros de aquellos consejos de gobierno pero no fuimos corresponsables de la gestión posterior que de aquellas reclamaciones de la unión europea se fueron haciendo

ocultadas disimuladas o mal respondidas por parte de las diferentes diputaciones en cualquier caso aquello se tuvo que salvar gracias a la intervención del abogado del estado

pero es con los hechos donde se demuestra de verdad el verdadero apoyo el movimiento como se suele decir se demuestra andando
y nosotros ese recorrido ya lo hemos hecho eskerrik asko pastor jauna egibar jauna zurea da hitza

entre otros nos llevó la ugt de la rioja y previamente muchos abogados del estado recurriendo todos los incentivos pero bueno

y en el contexto de una negociación como ha sucedido siempre

se conseguían cosas incluso compromisos como los referidos

porque el fondo de compensación interterritorial es que no lo cifra el parlamento vasco son los presupuestos generales del estado

entonces es una carta no asumida pagamos el seis coma veinticuatro la cifra

el congreso de los diputados y pagamos el seis coma veinticuatro podemos hacer también otros números

cuál es la inversión de ese estado que también gobierna aquí en cifras reales y creo que el saldo es positivo para esta comunidad y creo que lo mismo que se dice que si estamos

eso también hay que ajustar hay que ajustar pero para eso hace falta que la comisión mixta se reúna que no se dilate en el tiempo indefinidamente

si el gobierno español no se siente concernido y no se siente vinculado para no solamente recoger sino respetar el carácter evolutivo del concierto económico ajustándolo y actualizando cuando procede pues es evidente que está relegando y está gestionando también unos tiempos políticos

la razón por la que en este momento se embiste contra el concierto y contra el convenio económico es

que evidentemente las comunidades autónomas no tienen financiación asegurada

contra la figura del concierto y el convenio vamos a poner las cosas en su sitio y a ver salvo upyd si de esta cámara podemos sacar una resolución conjunta unánime

debatir con usted pueda parecer debatir con un frontón no me resisto

explicarle cómo son las cosas en cualquier caso no me importa a mí que usted desprecie cualquier argumentación que el resto de parlamentarios y parlamentarias le ofrecen no solamente el gobierno ni el lehendakari lo que me llama poderosamente la atención es su contumacia

baina momentu honetan eskuartean dugun tresna ia hobetzerik dugun señor pastor efectivamente vayamos a los hechos

de euskadi esté haciendo pero no me negará usted ni los hechos que yo le he dicho antes también los vaivenes desde el año dos mil cinco hasta el año dos mil quince en el que estamos

en relación al propio concierto económico es decir que tengamos en cuenta todos los hechos aun admitiendo el esfuerzo que ustedes están haciendo porque durante las últimas semanas hemos asistido sí a un interés inusitado por el concierto económico y el cupo vasco

como tal concierto económico pero que deviene señor maneiro deviene

anteriores en el tiempo el régimen foral de los territorios vascos es una realidad anterior incluso a la construcción del estado español tal y como hoy lo conocemos

se produce por lo tanto en el año mil ochocientos setenta y ocho y desde entonces de forma ininterrumpida en los casos de los territorios de araba y navarra se ha mantenido el concierto y el convenio económico por cierto

en realidad solamente lo que se mantuvo

de mil ochocientos treinta y nueve y mil ochocientos setenta y seis por lo tanto cuando hablamos de los derechos históricos del autoorganización y el autogobierno de este pueblo

muy superiores a lo que hoy representa el concierto económico que se pretende cuestionar he dicho también que este sistema es un pacto político bilateral y que cuenta con el pleno respaldo de la ley así está contemplado en el denominado bloque de constitucionalidad y que ha sido avalado también por la unión europea que lo reconoce como acorde a la normativa europea y el tratado de la unión hablamos por tanto de un sistema enraizado en la historia que es singular pactado y que es legal segunda idea que quiero dejar clara es

implica como se ha dicho en primeras intervenciones un riesgo unilateral y es importante destacar que en base a esto euskadi siempre ha vivido de su trabajo

euskadi aceptó un gran riesgo porque en aquel momento la situación era muy complicada y la recaudación muy baja y desde entonces la primera obligación de euskadi es el pago del cupo a partir de ahí administramos nuestros recursos tercera idea importante euskadi es solidaria

del seis coma veinticuatro por ciento independientemente de cuál sea el nivel de riqueza relativa de euskadi en relación a españa mire hoy

una realidad que se pretende ahora cuestionar con una intención contraria a los intereses de euskadi a los intereses del bienestar y de la calidad de vida de la ciudadanía vasca y hoy que estamos mirando a un nuevo futuro económico social institucional y político que estamos tratando de actualizar y mejorar nuestro autogobierno adecuarlo a las nuevas realidades

al servicio de la defensa del concierto económico y del cupo que es mucho más que un instrumento de orden tributario y financiero en realidad se trata

que garantiza el bienestar de la sociedad vasca y es solidario

planteo tres iniciativas la primera es pedagógica defensa del concierto económico y su explicación no es algo que atañe única y exclusivamente al gobierno es una responsabilidad de todas y de todos en este sentido podemos seguir avanzando en tres ámbitos de actuación divulgar y propagar más el concierto económico en euskadi precisamente el mes que viene se presentará un libro redactado con este objetivo con el que ha colaborado el gobierno vasco explicar más y mejor el concierto económico fuera de nuestra comunidad una clara responsabilidad compartida en la que los partidos políticos de ámbito estatal que gobiernan en españa y otras comunidades autónomas

difundir internacionalmente el concierto económico y es una iniciativa en la que este gobierno se está empeñando en esta legislatura el ejemplo más reciente es el encuentro celebrado por el consejero de hacienda y finanzas con representantes

y les puedo garantizar por mi propia experiencia de la relación con todo el cuerpo diplomático que el sistema de concierto

es analizado como modelo de responsabilidad eficacia y solidaridad la segunda iniciativa es de carácter político

una propuesta para resolver las diferencias de interpretación en el abono del cupo actualmente vigente

con el nuevo gobierno español y la tercera iniciativa que propongo es de carácter institucional

una declaración institucional en defensa del sistema de concierto económico y cupo pongo a disposición este primer acuerdo de forma que pueda servir como base de

en las juntas generales de los territorios forales creo que merecen una consideración las juntas generales de los territorios forales y también después

pueden contribuir a poner de manifiesto que el concierto económico

no a todas y a todos sí casi a todas y a todos autogobernuari eta etorkizun politikoari begiratzen diogunean adostasuna eta